interes batzuei erantzun die las consecuencias de esta política de dispersión que acaba de cumplir ahora veinticinco años son ciertamente trágicas en este periodo de tiempo veinticuatro presos han muerto en prisión o fueron puestos

in extremis a las puertas de su muerte quiero recordar asimismo ante la nutrida presencia de representantes de miembros

las circunstancias a las que los propios familiares se ven injustamente sometidos relación de causa efecto consecuencia directa y sangrante

en esos interminables viajes en mil novecientos ochenta y dos rosa y arantxa amezaga de tolosa en mil novecientos noventa pili arzuaga isasi de laudio en el noventa y siete antxoni fernández

en el noventa y ocho jose mari maruri de zierbana un año después

en el dos mil sería rubén garate de otxandio quien fallecería en accidente

argi iturralde iñaki balerdi de lasarte en el dos mil tres como la irundarra

los familiares de leo esteban de tolosa rememoraron este mismo martes el décimo aniversario

de barañain o natividad junco de oñati en el bi mila zazpi supone la escalofriante cifra total

a consecuencia de los cuales más de un centenar ha resultado con de consideración el único objetivo de estas personas era es romper el destierro impuesto por medio de su esfuerzo y sacrificio romper el aislamiento con la fuerza del cariño a sus familiares presos porque

la separación anímica personal humana de su espacio vital

en qué ayuda la impotencia de ver a sus familiares de mayor edad a niños jugarse la vida en la carretera antes y después de cada visita de qué le sirve al preso la coacción semana tras semana día tras día

la política penitenciaria excepcional que los estados español y francés han aplicado a un colectivo concreto de presos no se ha proyectado conforme a criterios de legalidad por supuesto no se ha realizado en interés del preso no se ha preocupado por establecer justicia

otras necesidades de esa todopoderosa política antiterrorista de la cual las medidas penitenciarias son

como se ha repetido hasta la saciedad presos y familiares por tanto objeto de intereses espurios de intereses ilegítimos el trato dado a los presos de este colectivo ha priorizado esos intereses

condicionados a intereses políticos menos aún como se reconoce para incidir en otras personas en otros grupos

para conseguir mediante el chantaje a los presos lo que no se puede o no se quiere conseguir por otros medios más adecuados tales como el diálogo o la negociación

respetados en todo momento en todo lugar no se puede jugar con ellos manipularlos ni someterlos a cambalaches o contrapartidas y mucho menos se pueden establecer medidas o leyes que hagan de esos derechos papel mojado que los anulen en algo que todavía pretenda llamarse o reclamarse estado de derecho politika honek ez du legedian edo nazioarteko gomendio eta printzipioetan inolako

el parlamento vasco muestra su apoyo a la política penitenciaria llevada acabo por el gobierno de españa como uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo hemen aitorpen bat respetuosa con los derechos humanos hemen gezur bat

señor lehendakari nos encontramos ante una nueva iniciativa parlamentaria de eh bildu en relación a los presos de eta en esta ocasión para rechazar la política de dispersión que se aplica a los presos de eta convendría realizar algunas aclaraciones previas ante las mentiras habituales que rodean a eso que se llama la izquierda hay que decir que la dispersión de los presos de eta es perfectamente legal hay que decir que la dispersión de los presos de eta no vulnera ningún derecho fundamental ni de los presos de eta ni de sus familiares o amigos hay que decir que la dispersión de los presos de eta

con los derechos humanos hay que decir que no hay ninguna ley donde se recoja que los presos tengan derecho absoluto a cumplir condena cerca de su domicilio el acercamiento es una posibilidad pero no es una obligación para la administración

la dispersión es un derecho que tiene la propia administración precisamente de situar a los presos allí donde le convenga allí donde nos convenga

a una mayoría de los ciudadanos la dispersión es la forma que tuvo y que tiene el estado de defenderse de la amenaza terrorista

y fortalecían se retroalimentan y se fortalecen y la dispersión de los presos de eta tiene todo el sentido del mundo en el momento presente

y sigue de un modo u otro vigilante y por lo tanto amenazante dicho esto ustedes exigen al resto

y al gobierno de españa todo tipo de medidas que favorezcan de un modo u otro a eta

y a la estrategia de eta esto es lo habitual en el mundo de eh bildu exigir todo

al gobierno vasco exigir todo al gobierno de españa según ustedes hay que excarcelar a los presos supuestamente enfermos porque ustedes lo dicen según ustedes hay que excarcelar a los presos que han cumplido parte de la condena según ustedes hay que excarcelar a los presos mayores de setenta años según ustedes hay que acercar primero y luego excarcelar

según ustedes hay que acabar con la incomunicación según ustedes no hay que detener a los delincuentes si se detiene a los delincuentes

todas y cada una de las exigencias de la banda terrorista hay que recibir con honores a sus enviados especiales y aplaudir entregas de armas sin armas hay que permitir los homenajes a los presos de eta

porque ustedes lo dicen según ustedes hay que poner en suspenso la política antiterrorista y hay que suprimir la audiencia nacional en fin todo

que pueden resumirse en la principal hay que hacer todo lo posible para garantizar la impunidad de eta este digamos que es

al fin y al cabo defender la máxima impunidad posible para los presos de eta según ustedes los que nos oponemos a sus reivindicaciones

ustedes plantean reivindicaciones envueltas siempre en falsedades de todo tipo reivindican derechos

por cierto después de vulnerar o ayudar a vulnerar derechos que sí que existen como es el derecho a la vida se inventan derechos que no existen ustedes exigen al estado de derecho todo pero ustedes no realizan

autocrítica siguen sin condenar a la banda terrorista siguen sin exigir a la banda terrorista su disolución definitiva e incondicional

incapaces de decir que eta no tuvo nunca ningún sentido incapaces de pedir públicamente perdón incapaces de decir nos equivocamos incapaces de reconocer el daño causado ni ustedes ni los presos

sin embargo no exigen a la banda terrorista su disolución definitiva e incondicional no piden públicamente perdón por sus acciones criminales

pendientes de resolución no reconocen el daño causado y no dicen que nunca tuvo ningún sentido nada de lo que hicieron de esto hace el mundo que rodea a eta al revés siguen en sus trece y pretendiendo plantear un pulso al gobierno de españa y al estado

defenderemos el estado de derecho y por eso votaremos en contra de su iniciativa nosotros hemos planteado una enmienda de totalidad a esta iniciativa que

y resume los principios fundamentales que entendemos nosotros debería basarse una política penitenciaria la política penitenciaria una iniciativa que ya

nosotros proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa a que en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo y para evitar cualquier tipo de impunidad o injusticia

la ley general penitenciaria y el reglamento penitenciario de modo que se condicione la obtención de cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento por parte del preso de todos los requisitos legalmente establecidos sin ningún tipo de excepción es decir desvinculación definitiva de la banda terrorista petición de perdón

de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades y la justicia que permita resolver

pendientes de resolución esta es la iniciativa que nosotros defendemos esta es la política penitenciaria que nosotros defendemos los presos de eta

víctimas como ustedes siempre los presentan las víctimas básicamente somos la sociedad vasca y especialmente evidentemente las víctimas del terrorismo nada más y gracias

gracias señora presidenta señorías la política penitenciaria que defendemos los socialistas es suficientemente conocida porque la explicó

y por tanto hoy seguiremos defendiendo esa misma política la que recoge nuestra enmienda a la iniciativa de eh bildu y seguimos defendiendo lo mismo porque creemos que ese es el camino para poder afrontar con rigor este debate un debate que por otra parte

pero nosotros insisto seguiremos defendiendo que es necesario que este parlamento pida a los presos condenados o a la espera de juicio por delitos terroristas que de manera personalizada rompan decididamente y de forma pública con eta

su reinserción y poder recuperarlos para la vida democrática

como hemos dicho en otras ocasiones que reclamemos porque somos partidarios de una política penitenciaria consensuada dinámica y flexible basada en la reinserción

seguimos defendiendo que hay un camino ya trazado que ha dado resultado

no va a ser problema de nombre que permite que los presos puedan recorrer el camino para la reinserción y

sin embargo yo quiero hoy señor arzuaga reconocer que usted

en esta intervención no ha hablado de presos políticos y es bueno que así lo haga que reconozca

insistiré en que el futuro de los presos está en primer lugar en manos de los presos

porque son ellos los que tienen que seguir tomando decisiones en el camino que he indicado

en pedirle que les animen para que lo hagan porque seguramente si eso se hace será
mucho más rápido y más fácil abordar la cuestión que usted nos ha traído aquí nada más muchas gracias eskerrik asko ares jauna

egun on guztioi lehendakari jauna egun on señorías el artículo veinticinco de nuestra constitución de la constitución española
contiene el mandato que inspira el conjunto del ordenamiento jurídico español el mandato que

español en el sentido de que la pena privativa de libertad las penas privativas de libertad

en todo caso para favorecer la reinserción y la reeducación de los reclusos ese es

inspirador de nuestro ordenamiento jurídico y para ello para dar cumplimiento a ese principio fundamental un principio constitucional

del penado de la persona privada de libertad para que a través de un recorrido

para que a través del cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley

en el grado de cumplimiento de su pena y estos requisitos o estos condicionamientos legales son y me lo han oído decir en alguna otra ocasión y creo que es importante recordarlo de los más avanzados en derecho comparado de la unión europea

no hay una legislación en materia penitenciaria en europa más avanzada que la española en materia de reinserción y de reeducación

la realidad por mucho que se quiera ocultar es que a lo largo de toda la historia la banda terrorista eta

para hacer precisamente ese recorrido individualizado fue una decisión estratégica de la banda terrorista eta impedir expresamente que lo miembros de la banda detenidos juzgados con forma de legislación y encarcelados

individualizadas bien fuera

bien fuera a través de la presión social a su entorno o como ustedes bien saben a través de la purga interna contra aquellos o aquellas

y acogerse a esa legislación que como antes les decía es de las más avanzadas de europa en materia de

por eso en un momento determinado ante esa estrategia calculada definida y aplicada con toda la contundencia por la banda terrorista eta que llevó incluso a asesinar a miembros de su propia organización que se habían acogido a medidas de reinserción el gobierno de entonces

además compartida por una mayoría del arco parlamentario entonces

social y política en euskadi también aplicó lo que hoy se denomina y lo que debatimos como política de dispersión que lo que pretendía era precisamente romper eso

que la banda terrorista eta ejercía sobre sus presos un control que les impedía tomar libremente decisiones individualizadas y que incluso una vez juzgados y encarcelados les sometía

eta la política de dispersión pretendía por supuesto y pretende romper ese control por parte de la organización terrorista sobre sus presos

y una capacidad a los reclusos para tomar sus propias decisiones alejados despojados

para tomar sus propias decisiones y de esa manera también romper el llamado el autodenominado por parte de la banda terrorista eta

siempre ha tenido sobre sus miembros una vez que han sido encarcelados y hoy lo que ustedes usted señor arzuaga ustedes

se niegan a aceptar es algo fundamental que creo que es importante que lo entiendan porque ayudará mucho seguro al debate y ayudará mucho también a entender por dónde van a ir las cosas en el futuro algo que a nuestro juicio es clave

el gobierno de españa no va a aceptar la interlocución de ningún colectivo de ninguna banda para hablar de política penitenciaria

combatió combate y ha vencido a una banda terrorista pero nuestra legislación penitenciaria

reinserta y trata a individuos no a colectivos ni a bandas terroristas por eso

fundamental y es que la política de dispersión existirá mientras existan bandas y organizaciones que quieran utilizar a sus presos como un colectivo y que quieran utilizarlos como una parte más de su estrategia existirá

una estrategia pensada diseñada y ejecutada para utilizar a individuos que han sido encarcelados como parte de una estrategia global de presión

de macos en este caso es una estrategia

es una estrategia que alimenta y que da oxigeno la propia banda terrorista eta con su negativa a disolverse de una vez por todas

expresadas por no sé quién no la marca el eppk no la marca ningún colectivo la marca el estado de derecho la marcan los gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos y la marca el interés general del estado

los presos de eta no son tan singulares esta es una política como usted sabe que se aplica a las formas más graves de delincuencia organizada sea cual sea su expresión no solo a los presos de eta como le digo

mafias narcotraficantes traficantes de seres humanos etcétera etcétera

la política de dispersión nació por eta y morirá con eta la política de dispersión nació

de eta quien mantiene la política de dispersión

en utilizar a los presos como una estrategia más incluso una vez que han sido derrotados como organización terrorista es la tozudez de eta en no disolverse súmense ustedes a la exigencia mayoritaria de los vascos a eta esa exigencia que le dice a eta que se disuelva una vez que no exista una banda terrorista que quiera controlar a individuos

por haber cometido delitos la política de dispersión acabará está en el tejado de la banda terrorista eta disolverse y permitir que los presos que militaban en esa organización puedan tomar sus decisiones libremente

acogerse a ese recorrido que nuestra legislación penitenciaria permite para evolucionar en el cumplimiento de sus penas muchas gracias

al señor maneiro le quiero decir sin demasiada esperanza ya que

presionar o coaccionar a los presos para conseguir otros fines otros fines bastardos otros fines espurios

y si además esos fines que se buscan son políticos es un chantaje político conozco

su catálogo de requisitos catálogo que por otra parte parece tener también con el señor sémper y tal vez con el señor ares que hoy se fijaba en los términos que empleo o que no empleo en cualquier caso en el libro

empleo y que se le hacía también a este debate reiterativo

la última decisión que al respecto se adoptó en otras circunstancias con otra

situaciones que todos conocemos en las cuales se dio otra decisión en el sentido absolutamente opuesto

que ha tenido el señor sémper en la cual decía una cosa y absolutamente su contraria ya que ha venido a justificar una política penitenciaria que usted reivindica

como un dechado de virtudes le quiero preguntar cuál es el rendimiento que ha dado porque si yo veo un rendimiento real de esta política

presos que han muerto en instituciones que ustedes administran

sometidos a una política que usted se jacta en mantener glorifica porque supuestamente podría tener algún tipo de repercusión algún tipo de rédito en otros ámbitos una política violenta que deberá asumir tanto en su diseño como también en sus consecuencias igualmente violentas decía que la nuestra es una estrategia a ninguna parte bueno pienso que el restablecimiento de derechos fundamentales la salvaguarda

sin duda no es una estrategia a ninguna parte en qué quedamos la política penitenciaria es una aplicación ordinaria o normal de la constitución del ordenamiento que usted se refería o es un pilar de política antiterrorista

excepcional por motivos excepcionales y para circunstancias excepcionales y un poco en la línea de lo que les

excepcional le obliga ahora a mantener esa política le voy a decir mire no hay una política penitenciaria excepcional hay dos

excepcional que se aplica a aquellos presos que han confrontado de una manera u otra el estado y la política excepcional que se aplica

a aquellos que han actuado protegidos y vinculados por el estado la política penal que ha arrancado pruebas por métodos ilegítimos con la voluntad de adjudicar una

penal que ha buscado cualquier rendija para evitar el castigo la política penal de la venganza

la política penitenciaria del cumplimiento íntegro frente a la política penitenciaria del indulto

y la política penitenciaria de la puerta de atrás siempre abierta dos políticas que equidistan en términos opuestos de una política ordinaria aquella basada en la proporcionalidad de la pena

basada en todos sus derechos fundamentales que les asisten

no cejaremos hasta traer a ambas políticas excepcionales tanto la una como la otra a la aplicación en términos

de los presos y de todo lo que rodea ese mundo bueno lo cierto es que hasta hace más bien poco

señalara a otro representante político democrático con el calificativo de irresponsable

con el calificativo de enemigo de euskal herria lo cierto es que podía tener como consecuencia el asesinato de ese representante político bueno

en todo caso durante las acciones criminales de eta hubo

que actuaron de manera digna y responsable en defensa de la democracia y evidentemente ahora que eta sigue sin desaparecer pero que ya

pues vamos a seguir haciéndolo por mucho que ustedes nos acusen de irresponsables

o de todo lo que ustedes consideren vamos a seguir siendo enteramente libres para defender postulados y objetivos que son perfectamente

una mayoría de ciudadanos decentes de euskadi y del conjunto de españa

qué objetivos bastardos defiende upyd el fin de eta es un objetivo bastardo

bastardo que no haya ningún tipo de impunidad es un objetivo bastardo que se garantice que haya justicia para la sociedad decente para la sociedad democrática

es un objetivo bastardo son objetivos perfectamente democráticos que vamos a seguir defendiendo como hemos defendido en el pasado sin ningún tipo de miedo

sus insultos o sus amenazas por lo tanto objetivos bastardos ninguno objetivos decentes y objetivos democráticos señor

lo que considere efectivamente pero en todo caso el gobierno de españa tiene la obligación absoluta de defender el interés general y es lo que nosotros exigimos al gobierno de españa que defienda el interés general y que ponga o mantenga todas las políticas a su alcance respetuosas todas ellas con los derechos humanos para lograr ese objetivo definitivo de la derrota definitiva e incondicional de eta por lo tanto el gobierno de españa tiene como objetivo defender

y el logro definitivo del deseo de la mayoría de los ciudadanos de los demócratas de lograr la derrota definitiva e incondicional de eta por lo tanto

en el debate de hoy y voten ustedes lo que voten el objetivo del gobierno tiene que ser ese y la dispersión tiene todo el sentido del mundo en el momento actual existe una banda terrorista que sigue sin disolverse y que pretende controlar

a día de hoy también como en el pasado la política de dispersión tiene todo el sentido del mundo es perfectamente legal y es perfectamente respetuosa

un deseo nosotros planteamos un deseo también fundamental en este asunto que el partido nacionalista vasco eleve su listón

a eh bildu y a todo lo que rodea a eta esto es lo que debería hacer el partido nacionalista vasco como principal partido político de euskadi

y no lo hace usted debería recordarles a aquellos señores que siguen sin condenar a eta usted debería recordarles que eta sigue sin disolverse que está

y que está vigilante esto es lo que usted debería defender como representante de un partido político democrático señalarles a aquellos señores qué es lo que deberían hacer para poder tener legitimidad democrática centrarse en aquellos pero no para apoyarse en ellos sino precisamente para recordar que siguen sin cumplir

la decencia de la sociedad democrática la justicia

en eso debería centrarse usted en lugar de en fin volver a darles aire y actuar como si fuera un partido político como los demás cuando insisto siguen sin condenar a eta siguen sin exigir

que el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco pudiera estar a la altura de las circunstancias y defienda por encima de todo los más básicos principios democráticos gracias

le ha molestado que yo reconozca que al menos en lo que hace referencia

ustedes han evolucionado lo reconocía como algo positivo porque se lo veníamos exigiendo estas y otras muchas cosas y por lo tanto cuando lo hace no tenemos ningún empacho en reconocerlo desde esta tribuna en fin si a usted le resta credibilidad

lo lamento pero ese era el objetivo de mi intervención referida a esa cuestión

todo el mundo tiene derecho a cambiar incluido usted que lo hace pocas veces

porque le recuerdo que la política de dispersión se pactó por el gobierno de españa con ustedes ahora decir

tienen todo el derecho a hacerlo pero al menos hay que hacerlo con un cierto rigor porque ustedes van a votar según usted ha anunciado que la política de dispersión que se aplica no es conforme a las recomendaciones

porque en su origen vulnera los derechos humanos de los presos y sus familiares desde cuándo

dispersión con los gobiernos de españa también era contraria a las recomendaciones internacionales también vulneraba los derechos humanos

tienen derecho a cambiar tienen derecho a acordar la política de dispersión y ahora a decir que hay que hacer otra cosa pero un poco de rigor porque ustedes van a votar esto que le acabo de leer

no era contraria a los principios internacionales ni vulneraba

el problema es que en política hay que cambiar cuando uno quiere hay que mantener rigor

el único portavoz que soy es de mi grupo parlamentario lo que hecho ha sido reproducir recordar cosas que ya se han dicho

y que han manifestado otras personas lo que pasa que a veces la política

y han sido fijadas en reiteradas ocasiones también en esta materia y es importante al menos

cuáles son las reglas del juego y qué es lo que unos y otros pedimos porque usted señor

tiene derecho a evolucionar tiene derecho a cambiar tiene derecho a equivocarse a retroceder sobre sus pasos pero claro cuando

no estuvo ni en el diseño o no ha estado ni en el diseño ni en el desarrollo ni ha aceptado recortes en derechos humanos en materia penitenciaria eso lo podemos afirmar cualquiera de los que estamos aquí pero ustedes

sí estuvieron en el aplauso político a la política de dispersión estuvieron en el aplauso político a la política de dispersión y obviamente claro que sí como dice el señor ares tienen ustedes derecho a cambiar

no a cambiar la historia porque ahora les pueda interesar a ustedes mantener otra posición política

cuando afirmó que la dispersión carcelaria de los presos de la banda terrorista eta es buena

y además porque rompe la estrategia de eta de colocar en punta de lanza de sus reivindicaciones a sus militantes encarcelados creo que fue el señor arzallus en el año mil novecientos noventa también

y de imponer los criterios de la organización el gobierno cayó en la cuenta

una mayor autonomía de cada preso porque si son más controlables por el comisarios político de turno

múltiples manifestaciones de importantes de notables dirigentes del partido nacionalista vasco en el aplauso

cuando la política de dispersión permitió que numerosos presos de eta se acogieran a medidas de reinserción individualizada eta

a sus familiares y a ellos y les obligó a no aceptar una estrategia de reinserción individualizada porque no podía permitir

de macos esa es la realidad y señor arzuaga debe de ser usted un poco más humilde hablando de derechos humanos yo creo que ya

yo ya me conformaría viéndole ser un poco más humilde porque si tenemos y se lo explico

adecuada si tenemos una legislación avanzada una legislación penitenciaria avanzada en materia de reinserción la política penitenciaría

a favorecer que los presos puedan acogerse a esa legislación avanzada y por eso le decía que el estado de derecho combate

pero que una vez encarcelados no tienen privilegios por haber pertenecido a una banda terrorista y eso es lo que deben de entender

por haber pertenecido a una banda terrorista señor

y mire yo entiendo su situación la entiendo la suya

en relación con los presos encarcelados la entiendo hoy en las cárceles ven que ustedes pisan moqueta les ven que gobiernan en el ayuntamiento de san sebastián

en la diputación foral de gipuzkoa que gobiernan en numerosos ayuntamientos les ven institucionalizados quienes se creyeron lo de la revolución y que les llevó a poner bombas y a utilizar pistolas

que está en una descomposición evidente que se acabó que todo aquello por lo que utilizaron el terrorismo no ha servido para nada más que para generar dolor y pare encarcelarles a ellos

que mantener la bandera de determinadas reivindicaciones que son de imposible cumplimiento la tozudez de la banda terrorista eta unida a su tozudez para sumarse a la mayoría de la sociedad vasca que le reclama a eta que sea cuanto antes

mantiene la necesidad de seguir combatiendo a eta con todas las herramientas que el estado de derecho nos proporciona téngalo claro mientras la banda terrorista eta siga existiendo se niega a disolverse mientras sigan queriendo utilizar a los presos como un colectivo como

un elemento más propagandístico sémper amaitzen joan que es para lo que utilizan ustedes a los presos

propagandístico y político su situación penitenciaria en este caso en el cumplimiento de la pena en lugar del cumplimiento de la pena

cambien de una vez exijan a eta que se disuelva que eta se disuelva y muchas cosas se transformarán

y de la banda terrorista eta no de quienes siempre hemos utilizado una herramienta como es

y es verdad la traducción es correcta el partido nacionalista vasco

ni en el diseño ni avaló ni a sostenido en el tiempo ninguna estrategia penitenciaria que pudiera vulnerar derechos de los presos es así no la hemeroteca a la que se ha referido es un corta pega de abc

seguro le apuesto a que es de abc puede decir lo que quiera incluso manipulando el lenguaje como está manipulando claro este argumento trasladado a la otra bancada

también habría que decirle al pnv que participó en el diseño de eso

que en origen lo que el partido nacionalista vasco hace es a petición de los presos de eta que están en herrera de la mancha y alcalá meco

trasladar al ministerio correspondiente

la petición de esos presos que pedían que se les

separara incluso en la misma prisión decían que había posibilidades que había trescientos setenta presos en esas dos cárceles

después se ha manipulado evidentemente con

torticero esto de dispersión unido a alejamiento en contraposición a lo que podía ser perfectamente una separación

en módulos o en cárceles cercanas a euskadi y permitir lo que

iniciaron algunos y hoy el colectivo de presos

ha decidido eso es lo que estaba

y el señor múgica y los que le siguieron incluido el director de prisiones entonces lo que hicieron es

la dispersión al alejamiento como un castigo y ustedes las dos formaciones políticas y me he referido al año

la política penitenciaria y es literal cójase el pacto antiterrorista punto cinco concebida como instrumento de persecución de la organización terrorista

ustedes lo que le han otorgado a eta es esa excepcionalidad también política que tiene asociado o tiene asociada esa excepcionalidad también legal

bueno vamos a colocarnos en el presente a ustedes no les parece relevante el hecho de que eta haya anunciado el cese definitivo abandone definitivamente las armas no hay razón suficiente para despojar a la legislación vigente de esa excepcionalidad que le ha acompañado y le ha caracterizado a la política penitenciaria

no se puede trasladar eso al ministerio no es lógico no es lógico que la política penitenciaria

porque ese objetivo de lucha contra eta ha desaparecido esa excepcionalidad que ha revestido a toda la legalidad penitenciaria no se puede despojar eso es lo que estamos pidiendo

la vía de la reinserción o resocialización con los condicionantes que existían en aquel momento

que en este momento por las circunstancias que sean y apúntense todos los tantos que quieran todos y cada uno de los presos de eta están dispuestos a hacer el mismo recorrido merece la pena o no el que esa legislación se adapte a la nueva realidad nosotros creemos que sí y por eso vamos a votar afirmativamente

europar parlamentuak argitaratu duen zuzentarauan ikus dezakegu decía que hay una directiva europea la directiva dos mil catorce barra veinticuatro del parlamento europeo y del consejo del veintiséis de febrero del dos mil catorce que

puedan priorizar los aspectos sociales y medio ambientales en las licitaciones y no solamente el precio más competitivo eh bildutik ulertzen dugulako

nosotros no vamos a apoyar la iniciativa de eh bildu nosotros vamos a votar finalmente nuestra propia enmienda de totalidad no hemos llegado a ningún acuerdo con ningún otro partido político bueno hemos leído la iniciativa de eh bildu

pues las juntas generales de gipuzkoa aprobaron efectivamente el diecisiete de julio

sobre cláusulas sociales como consecuencia en todas las obras públicas promovidas por la diputación las empresas deben cumplir el convenio laboral correspondiente al territorio y además se dice que se garantizan algunos otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo efectivamente la norma foral está vigente pero la autoridad vasca

su suspensión provisional como medida cautelar nosotros no vamos a instar a la autoridad vasca de la competencia a abandonar la vía judicial

no vamos a apoyar tal cosa entendemos que tendrá sus argumentos para hacerlo

le instaríamos posiblemente a su propia disolución disolución de la autoridad vasca de la competencia pero

sino fundamentalmente porque pensamos que es uno de esos organismos superfluos autonómicos que bien podría ser suprimido en todo caso efectivamente este no es el debate además

del tribunal superior de justicia del país vasco que dice lo que dice y a partir de ahí la parte propositiva instar a la autoridad vasca de la competencia a que abandone la vía judicial

con el argumento de que la defensa de los derechos de los trabajadores debe prevalecer sobre el principio competencia yo no creo que sea el asunto sobre el que deba debatirse de hecho no es esto lo que eh bildu nos somete a votación es decir si existe ese argumento de que la defensa de los derechos de los trabajadores debe prevalecer sobre el principio de competencia sino en concreto la posibilidad de instar a la autoridad vasca de la competencia a abandonar la vía judicial contra la norma foral y nosotros ya hemos dicho que no vamos a hacerlo creo que el asunto importante a debatir o sobre lo que nosotros queremos debatir o aquello que nosotros queremos plantear es

de introducir determinadas cláusulas sociales en los pliegos que aprueben las distintas instituciones públicas respetando en todo caso la legalidad vigente

la máxima seguridad jurídica yo creo que este es el asunto de fondo y sobre la cuestión creo que hay que hablar de manera lo más rigurosa posible es decir posibilidad de introducir cláusulas sociales pero teniendo en cuenta cuáles son los límites establecidos la legalidad vigente y garantizando la máxima seguridad jurídica se definen las cláusulas sociales como la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública bien como requisito previo

o como una obligación inherente al contrato de forma

debe vincularse la contratación con la cohesión social pudiendo abordarse diversas temáticas desde la contratación pública responsable discapacidad

calidad en el empleo o inserción socio laboral entre otros no podemos olvidar que cada vez que una autoridad pública adjudica un contrato está produciendo un impacto

por lo que resultaría incongruente obviar sus consecuencias sociales en nuestra opinión la contratación pública debe salvaguardar sus principios básicos

y no discriminación pero no debe obviar otros principios objetivos

compaginarlos no solo es lícito sino que es coherente con los principios rectores del ordenamiento eficiente sinérgico y además rentable

que defiende y garantiza y posibilita la introducción de cláusulas sociales en los contratos públicos distintas instituciones en el ámbito español están introduciendo ya distintas cláusulas sociales en sus contrataciones diferentes comunidades autónomas ayuntamientos están dando esos pasos en los últimos tiempos la contratación pública es un instrumento más de la política pública y por lo tanto

todos los aspectos de esas políticas públicas a la hora de asignar el contrato público o bien las subvenciones públicas deben tenerse en cuenta el precio y la calidad del servicio pero también otros aspectos como los criterios sociales que incentiven conductas socialmente deseables y que contribuyan a penalizar aquellas que no lo son se trata por lo tanto de que existan criterios sociales

conductas socialmente deseables y que penalicen conductas socialmente indeseables

prácticas abusivas o directamente comportamientos ilegales y es ahí donde se inserta y tiene sentido nuestra enmienda de totalidad en la que proponemos que este parlamento inste al gobierno vasco y al resto de las instituciones a que en los pliegos que se aprueben para la licitación

se incorporen cláusulas sociales que por un lado valoren de forma positiva las socialmente responsables y por otro lado se penalicen

indeseables entre las actividades socialmente responsables el cumplimiento del convenio colectivo los contratos indefinidos la inserción de personas con discapacidad objetivos medioambientales entre otros y entre las conductas y actuaciones socialmente indeseables condenas por tráfico de influencias condenas por fraude fiscal y sanciones de la inspección de trabajo

proponemos que todo eso se tenga en cuenta

las actuaciones socialmente responsables y se penalicen las conductas y actuaciones

indeseables digamos que guarda cierta relación o bebe

de una enmienda que hace casi un año se aprobó en este parlamento en concreto en la diputación permanente en el mes de julio del año dos mil trece y que fue apoyada por el partido socialista el partido nacionalistas vasco y upyd donde se decía que el parlamento

el hecho de que las condiciones laborales del personal de las empresas concurrentes estén reguladas sobre la base de un convenio colectivo por lo tanto y por todo esto nuestra enmienda de totalidad la iniciativa no podemos considerarla como apoyable y tampoco las demás enmiendas ni la enmienda del grupo nacionalistas vascos ni tampoco la del grupo socialistas porque el primero de sus puntos pretende que instemos a la autoridad vasca de la competencia creo que esta autoridad hace la labor que le corresponde en función de sus funciones

y por otro lado recuerda un acuerdo de este parlamento del diecisiete de octubre del dos mil trece en aquella ocasión

del partido socialista y eh bildu puesto que upyd y el partido popular nos abstuvimos en este punto obviamente nosotros volveríamos a abstenernos

se inscribe en un debate que ha tenido ya bastante ediciones aquí y que

hoy no acaba porque va a tener más ediciones seguramente ustedes plantean en la iniciativa instar a la autoridad vasca de la competencia a que retire

nosotros vamos a hacer una intervención de tipo general que tiene que ver con el hecho de si los convenios colectivos porque quiero empezar por decirle al señor maneiro que no está atento está en otra cosa pero

no es un tema de discusión las cláusulas sociales se pueden incorporar

está perfectamente admitido y hasta en el informa que hace la autoridad vasca de la competencia así lo reconoce por lo tanto debatir sobre si la inclusión de cláusulas sociales

es adecuado o no es un poco ocioso porque está reconocido como que es así en cambio ofrece más dificultades

la inclusión en los pliegos de condiciones del sometimiento a los convenios colectivos de aplicación nosotros como sabe usted señora zulaika mantenemos una posición que es la de entender

en la contratación pública hay que seguir respetando el derecho positivo es decir

y se lo digo por qué el artículo ochenta y dos del estatuto de los trabajadores dice los convenios colectivos regulados por esta ley obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia cabe suponer por tanto

la norma es clara es de aplicación en todo su ámbito temporal y espacial por lo tanto no cabe dispensa alguna sin embargo sabemos que el gobierno vasco y el partido que lo apoya no está en esta labor cuando redactó su informe de cumplimiento de mandatos parlamentarios en lo atinente al diecisiete de octubre al que planteábamos entonces

que no se puede cumplir porque la autoridad vasca de la competencia efectivamente y la abogacía del estado lo habían recurrido usted ya ha recordado que en la petición de medidas cautelares a la abogacía del estado los tribunales le dijeron que no y eso en un contencioso ya es bastante nosotros

respetamos la independencia de la autoridad vasca de la competencia pero desde luego

sus planteamientos no los compartimos entre otras cosas porque uno de los fundamentos es la directiva dieciocho barra dos mil cuatro que resulta que esta de enero

la deroga expresamente por lo tanto los fundamentos jurídicos o parte de los fundamentos jurídicos en los que se ampara el recurso de la autoridad vasca de la competencia

respetando todo punto de vista por supuesto entendemos que ya la autoridad vasca de la competencia ha quedado por lo menos en esos fundamentos jurídicos superada por una directiva

la dos mil ocho barra catorce

la directiva actual que dice esta resolución yo en una pregunta que le hice al gobierno lo leí las preguntas como saben ustedes se hacen en un trámite muy breve de poco tiempo lo tuve que leer atropelladamente

que no era cierto lo que yo estaba leyendo lo voy a leer ahora con más tranquilidad porque hay tiempo para recordar como está en este momento

digamos europeo que hay que trasponer pero que es perfectamente aplicable a día de hoy

en el treinta y siete en aras de una integración adecuada de requisitos medio ambientales sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública

tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos de la legislación medioambiental social y laboral

tanto nacionales como de la unión así como de convenios colectivos siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el derecho de la unión

las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales

hagan ustedes un pliego de cláusulas generales en las que se incluya todo esto

entonces se pueden incluir y lo está habilitando una directiva europea y dice más

una falta grave del operador económico pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público como planteábamos en aquel acuerdo que se adoptó en aquella fecha más considerándoos el control del cumplimiento de dichas disposiciones en materia medioambiental social y laboral se realizará en la respectivas fases del procedimiento de licitación es decir a lo largo de toda la génesis

de contratación pública a saber cuando se apliquen los principios generales aplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos al aplicar los criterios de exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas la necesaria verificación a tal efecto se llevará a cabo con arreglo a las disposiciones pertinentes de la presente directiva

más ciento tres las ofertas que resulten anormalmente bajas

pueden estar basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico económico o jurídico cuando el licitador no pueda ofrecer una explicación suficiente

el rechazo debe ser obligatorio en los casos en que el poder adjudicador haya comprobado que el precio y los costes anormalmente bajos propuestos resultan del incumplimiento del derecho imperativo de la unión o del derecho nacional compatible con este en materia social medioambiental

es importante que se garantice que los subcontratistas cumplan las obligaciones aplicables a los ámbitos del derecho medioambiental social y laboral

pero es que luego además cuando llegamos al texto articulado y se habla de los principios de la contratación el artículo dieciocho

los estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de contratos públicos los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental social o laboral establecidas en el derecho de la unión el derecho nacional

aplicación en el lugar se pueden incluir en los pliegos de condiciones qué ocurre que el informe que hacía la autoridad vasca de la competencia es anterior a esta directiva nosotros ya entonces no estábamos de acuerdo pero si antes había dudas

lo que pasa es que si el gobierno efectivamente no está dispuesto a aceptar esta tesis que tiene verdadera fundamentación jurídica es porque realmente no está por la labor de aplicar los convenios colectivos y por extensión lógicamente se está burlando de la negociación colectiva que es lo que alumbra los convenios colectivos por mucho que digan que la defienden es decir al final obras son amores

en todo en territorio como lo dice el artículo ochenta y dos de los estatutos de los trabajadores aquí lo que va a ocurrir

que andando el tiempo un gobierno foral va a terminar teniendo la razón y el gobierno vasco va a quedar completamente

estas tesis de incluir los convenios colectivos en toda contratación pública está

eso se tiene que trasponer y finalmente está planteando cuál es el marco jurídico en el que se desenvuelven estas cuestiones

quedará en entredicho por no haber sido capaz incluso cumpliendo un mandato parlamentario que tiene efectivamente una percha perfecta para hacerlo

que quedan desvirtuados porque hay directivas que lo superan y bueno no voy a hablar de la abogacía del estado porque sabemos que recurre muchas cosas supongo que tendrá su fundamento defiende la legalidad vigente pero entendemos que ya el hecho de que las medidas cautelares no hayan sido aceptadas por los tribunales adelantan bastante lo que será el final de ese recurso

enmienda porque lo que plantea es cumplimiento de la legalidad con esta directiva cumplimiento del mandato parlamentario en coherencia con las cosas que aquí se deciden

askotan izan dugu hau jorratzeko aukera ganbara honetan pero a mí en esta ocasión me gustaría analizar la iniciativa presentada por eh bildu desde una doble perspectiva por una parte la primera el desconocimiento total y absoluto de la naturaleza jurídica y del funcionamiento de la autoridad vasca de la competencia y segunda el error mayúsculo en el planteamiento de la siguiente dicotomía respeto de los derechos de los trabajadores

que ustedes desconocen que la autoridad vasca de la competencia es un organismo autónomo

orgánica y funcional organismo autónomo que ejerce sus funciones con objetividad al ordenamiento jurídico y plena independencia de las administraciones públicas una cosa es que sea un organismo autónomo de la administración y otra cosa es

y no es eso porque se trata repito de un organismo independiente lo dice su artículo

como intuyo también desconoce las enmiendas que su compañero de partido el señor

presentó y defendió en la elaboración de la ley de la autoridad vasca de la competencia no fue una fueron hasta tres las enmiendas que eusko alkartasuna presentó y cito textualmente las justificaciones de las enmiendas para el mantenimiento de la autonomía e independencia de la autoridad vasca de la competencia entonces no llego a entender por qué

ustedes eusko alkartasuna defendía a capa y espada la independencia del organismo y hoy se empeñan en negar la mayoría de edad del mismo me parece que es una incoherencia total me imagino que ustedes conocen que la autoridad vasca de la competencia en el ejercicio de sus funciones

informes en contra sí en contra de la opinión del gobierno y les puedo poner hasta dos ejemplos

y el informe desfavorable emitido sobre el protocolo de colaboración de los puertos vascos siguiendo su lógica

el gobierno tendría que pedir a la autoridad que se aparte o que finalice con la instrucción de los expedientes porque claro no son de su agrado si el gobierno hubiera hecho eso

hay que recordar también como se ha dicho aquí que la norma foral guipuzcoana ha sido recurrida no solo por la autoridad vasca de la competencia sino que también por el abogado del estado

no se han puesto de acuerdo para presentar sus recursos teniendo en cuenta que analizan la realidad con diferentes gafas de ver uno analiza la legalidad y la autoridad analiza la defensa de la competencia ahora bien el abogado del estado sí que se rige por un estatuto jerárquico

y lo realmente curioso es que su grupo parlamentario en madrid amaiur no haya instado al gobierno del señor rajoy a que el abogado del estado retire el recurso planteado

señora zulaika por qué no han hecho ustedes lo propio en madrid

me responda entiendo que su único objetivo con la presentación de esta iniciativa

es bien distinto decía al principio de mi intervención que eh bildu incurre en un error al contraponer los derechos de los trabajadores frente a un sistema económico competitivo por qué tenemos que elegir entre una cosa o la otra

sus economías no son competitivas y los derechos de los trabajadores no están garantizados por qué lo plantean como términos antitéticos acaso no existe una economía donde además de ser competitiva se respetan los derechos de los trabajadores y trabajadoras

salvaguarda los derechos de los trabajadores está condenada a no ser competitiva y siguiendo con la defensa de los derechos de los trabajadores creo

no sea la mejor manera de defender los mismos están dando por supuesto que el convenio territorial guipuzcoano es mejor que por ejemplo

que puedan tener las empresas guipuzcoanas señor itxaso usted

instar directamente a la autoridad vasca de la competencia ahora bien también nos tendrá que explicar qué hace usted atacando la independencia de un organismo creado por un socialista para esto hicieron la ley para esto lo dotaron de autonomía no entendemos que ahora tampoco quieran ustedes reconocer la mayoría de edad de la autoridad y luego por otra parte

al hablar de la directiva usted dice

la tengo y yo también la he repasado lo que establece la directiva europea es como bien ha dicho usted en este caso que se puedan incluir cláusulas sociales en la contratación administrativa y que los estados y los poderes adjudicadores tienen que garantizar que se incluyan cláusulas sociales y medioambientales

pero siempre siempre y en todo caso respetando el derecho laboral vigente y respetando también el derecho de la unión

cada vez que la directiva hace referencia a los convenios colectivos

respetando siempre el derecho de la unión lo que no vale lo que no puede ser es que se quiera utilizar la contratación administrativa para saltarse por encima de la legislación laboral nos guste más

pero eso no se puede hacer no se puede utilizar la contratación administrativa con esos fines y respecto al apartado en el que usted vuelve a instar al gobierno al cumplimiento del

hasta en dos ocasiones que cumplir el mandato en estos términos plantea serias dudas de legalidad

de diferentes órganos de la administración usted acaba también de ser gobierno y yo no le he visto que haya puesto a la contratación administrativa o que haya querido poner a la contratación administrativa a los pies de los caballos tampoco seré yo

lo haga ha vuelto usted a mencionar aquí el debate entre pliegos de cláusulas administrativas generales y los pliegos particulares que hemos tenido en diferentes

no es el continente el problema en este caso es el contenido llamarle pliego de cláusulas administrativas generales que

tipo es lo mismo el problema insisto en el contenido hace mucho tiempo que nosotras sabemos que la contratación pública sirve para impulsar otro tipo de políticas

no nos van a dar lecciones en este tema les invito a que revisen los pliegos de cláusulas administrativas particulares del gobierno vasco y específicamente que revisen el apartado treinta y dos punto nueve que no lo voy a leer ahora

y es que los poderes públicos tienen que tomar las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de la legislación social y laboral aplicable en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios

velar porque se apliquen los convenios colectivos y en eso estamos en el pnv ahora bien insisto lo que no puede ser es que la contratación administrativa quiera utilizarse para regular las condiciones laborales saltándose la normativa laboral vigente

en que no nos gusta la reforma laboral pero por favor no pongamos a los pies de los caballos la contratación de toda nuestra administración besterik ez

muchas gracias señora presidenta yo cuando vi esta proposición la verdad es que pensé que todos nos equivocamos como me he equivocado yo antes a la hora de votar

tampoco le di demasiada importancia pero visto el debate

y algunas precisiones primero si como se nos ha explicado por la proponente el tribunal no ha aceptado la suspensión que pedía la autoridad vasca de la competencia no hay ningún motivo que impida a la normativa aplicarse por lo tanto no hay

hay por qué retirar el recurso sobre todo si algunos piensan que vamos que tienen todas las de ganar porque es muy legal el planteamiento que se ha hecho desde las juntas

y me voy a pronunciar en cuanto al fondo porque lo más lamentable no es el fondo de lo que se propone lo más lamentable probablemente sea la forma de la proposición que estamos discutiendo

es evidente que la unión europea y la legislación española permiten cláusulas sociales desde hace ya muchos años en los contratos de las administraciones públicas

que parece que es algo que aquí algunos confunden y

yo le tengo que decir una cosa es decir yo no sé por qué plantean ustedes que el mejor convenio colectivo del mundo y el que tienen que aplicarse a todas las empresas

y si alguien respeta tanto los convenios colectivos y su vigencia por qué no se pueden aplicar o por qué no pueden regir otros convenios colectivos

que afectan a empresas por qué hay que incumplir las leyes o sea no puedo entender

socialista y yo sí tengo que decir una cosa es decir el recurso que se ha planteado que hay varios por distintos motivos

por vulnerar la competencia pero por vulnerar la competencia por qué oiga porque qué pasa que las empresas vizcaínas

no pueden licitar en gipuzkoa o las alavesas no pueden licitar en gipuzkoa porque están sujetas a otro convenio

o el resto de europeas pero incluso las empresas guipuzcoanas que están sujetos a otro convenio distinto del de la construcción de gipuzkoa tampoco pueden licitar en gipuzkoa

salvaguarda de derechos sociales lo que parece es que es un articulo preparado ad hoc para que determinadas empresas guipuzcoanas solo algunas

adjudicarse las obras públicas en gipuzkoa y eso evidentemente contraviene toda la normativa europea y por supuesto toda la normativa española y por lo tanto nosotros en el fondo estamos en desacuerdo

este es un tema que nosotros trajimos aquí ya la legislatura pasada que nosotros ya se lo planteamos al gobierno socialista que en fin pues tampoco encontró la fórmula más adecuada para plasmarlo en las condiciones de los contratos o de la contratación del gobierno vasco y que parece que al señor itxaso tampoco le gusta cómo lo hacía su propio gobierno

y tampoco soluciona el problema de la subcontratación que es el problema porque si estamos hablando de verdad de lo que estamos planteando y lo que queremos pues puede venir una empresa

que aplican los convenios que tienen en su país europeo y se acabó la historia y se acabó la broma por lo tanto si el problema de fondo era ese

qué se hace impedir que empresas guipuzcoanas alavesas vizcaínas y del resto de europa y españolas no puedan acudir a una licitación en gipuzkoa

bien intencionado lo peor es que en un sistema democrático cuando se crean organismos de control organismos que teóricamente son independientes

cumplan también las leyes que los propios cargos públicos se han dado vengamos aquí

a cómo desde este parlamento se le quiere decir a un organismo independiente creado para eso que su función y obligación legal es acudir a los tribunales

a que vengamos aquí a decir que tiene que hacer lo que se le dice desde los órganos políticos

porque ese es el planteamiento que se está haciendo que por cierto es lo más antidemocrático que hemos oído desde hace mucho tiempo incluido en el punto anterior de este pleno

se creó como organismo autónomo orgánica y funcionalmente y dentro de sus funciones es sancionar a los privados e impugnar ante los tribunales a las administraciones públicas tal y como especifica el artículo tres punto cuatro de la propia ley de este parlamento y por lo tanto nos parece

pero desde luego democráticamente poco saludable que se nos venga a decir que a los órganos de control lo que hay que

por supuesto que nosotros velamos o entendemos sabemos que es un organismo independiente o que

y lo seguimos manteniendo pero eso sería en un mundo ideal

cómo se elige la presidencia y sabemos cómo funciona ese organismo además también

no entendemos muy bien cómo sigue perdón pensamos que el gobierno vasco

siempre que velar porque se cumplan las condiciones laborales por encima

situaciones de esclavitud y no se está haciendo así y si un organismo

pues no estaría mal que el gobierno vasco apostase porque así fuera tampoco tenemos muchas esperanzas de que así lo haga porque igual que no lo está haciendo con las contrataciones públicas tampoco lo está haciendo con el cumplimiento de las resoluciones que se han cumplido en este parlamento que parece que para algunas cuestiones tienen mucho vigor y prevalece

el tema de las reservas de mercado tampoco voy a volver a entrar hoy en ese debate no se están cumpliendo no se está haciendo nada por lo tanto

queda en evidencia y mientras tanto el partido que sostiene al gobierno

como digo el sometimiento al ordenamiento jurídico

sin dejar que otras y otros den esos pasos penalizando o intentando penalizar a quienes los están dando y sin cumplir como decía

sin aceptar dar nuevos pasos para proteger a los y las trabajadores públicos

y también poniendo ruedas y obstáculos a aquellas iniciativas que sí quieren dar pasos en esa dirección que quieren terminar con las situaciones de esclavitud que estamos viendo delante de nuestras narices hoy vemos como el pnv

la competitividad por encima como decía de cumplir con los derechos y obligaciones para con los trabajadores por encima incluidos también

o ayer cuando vimos cómo el gobierno vasco se posiciona en contra de una iniciativa legislativa popular una ilp que va en la misma línea de defensa de unas condiciones laborables dignas en obras y servicios públicos

el partido nacionalista además de negar que la directiva dice lo que dice lo negaba hoy y lo negó en su día del consejero de hacienda

lo que dice además de eso también inventa

hemos dicho que nosotros respetamos la independencia de la autoridad vasca de la competencia pero que no compartimos su criterio

el brocardo de opinio y iuris plena libertas es decir cada uno tiene su opinión nosotros no compartimos

pero además de no compartirlo ocurre que el recurso basado en un informe es anterior a la publicación de esta directiva y por lo tanto esta directiva pone blanco sobre negro cualquier duda interpretativa que pudiera caber

que efectivamente las condiciones de trabajo del lugar forman parte de los contratos públicos pero ahora esta directiva efectivamente esclarece todo claro refugiarse en planteamientos de bueno pero entonces como decía el señor damborenea es que si viene de bizkaia no le vuelvo a citar lo que dice

es convenios colectivos y el respeto a la normativa laboral a usted le sonará que la normativa laboral siempre se respetan las condiciones más beneficiosas el convenio

si hay condiciones más beneficiosas lógicamente el trabajador las puede invocar que mejoran las condiciones del convenio pero el convenio es una garantía es una garantía y además es justamente como he dicho antes la expresión de la negociación colectiva que a su vez es

es que cuando no se quieren hacer las cosas cuando se quiere sustraer en el tema de la contratación pública y se quiere llevar a cabo todos estos dicterios de desregulación se acude a cualquier tipo de argumentos pero lo cierto que eso es perfectamente encajable el sometimiento a los convenios colectivos y es que además no lo está diciendo este parlamentario que es que eso se ha dicho con mucha más amplitud y difusión en el parlamento europeo y por si fuera poco al día siguiente de su publicación la confederación europea de sindicatos

salieron a saludar el alumbramiento de esta directiva porque efectivamente ponía fin a todo este tipo de juegos de distracción

lo que hay qué es lo que ocurre que cuando no se quiere hacer una cosa no se quiere cumplir con el acuerdo parlamentario cuando no se quiere llevar a cabo este tipo de política social y

pero en el que se pide que se respeten las condiciones de trabajo y es que la directiva además

es que las condiciones de trabajo del lugar son imperativas no se pueden jugar con diferentes cartas por supuesto que como decía el señor maneiro él instaría a la autoridad vasca que se disuelva vamos a ver

lo mismo que con el derecho internacional que también es el cinismo y la hipocresía organizadas sin embargo

aunque pues en fin no sean la pureza inmaculada pero conviene que haya algo

que hay ventajismo en todas estas cosas y que se utiliza el término de competencia entre otras cosas para esta para arrumbar y orillar derechos laborales derechos sociales en definitiva

pero es importante que haya entidades que traten de alguna manera de poner orden de disciplinar conductas conseguir que efectivamente las reglas respondan a los fines o al destino para el que están creadas pero y esto no es un reproche a la autoridad vasca de la competencia al contrario entendemos su papel

no es ponerla en cuestión y en todo caso tampoco ponemos en cuestión las reglas de la competencia lo que décimos que ese es un juego en el que realmente el ventajismo tiene particular

por eso nosotros insistimos en que nuestra enmienda lo que trata es de conjugar el derecho el derecho europeo

que el acuerdo parlamentario aquí adoptado sea efectivamente un elemento que le lleve al gobierno a tenerlo en cuenta porque parece que respeta más a la abogacía del estado que a este parlamento en fin estas son las cosas que nos han animado a nosotros a presentar la enmienda no compartimos el planteamiento porque no instamos no instamos a la autoridad a que desista

de la nueva normativa reconsidere porque como he dicho estaba fundamentada
en una directiva que ha sido derogada nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

enviar a europa el impuesto de sociedades para asegurar que no habrá problemas con la normativa europea

por tanto utilizando su expresión forma parte de la normativa europea por lo tanto nos están pidiendo a nosotros que hagamos caso omiso de la autoridad del criterio de la autoridad que vela por la competencia en euskadi kontuz

muchas gracias señora presidenta yo la verdad es que no he entendido muy bien

la defensa de la iniciativa porque no se ha defendido la norma foral que supuestamente está recurrida a los tribunales

otros planteamientos y yo más que los recursos a los tribunales si fuera de bildu estaría más preocupado de que cualquier empresa sea guipuzcoana alavesa vizcaína española o del resto de europa

porque a lo mejor resulta que nos encontramos con que todo este asunto termina

en la que esta vez sí espero que si se produce esa multa sean los parlamentarios de bildu y los cargos públicos de bildu los que la paguen de su bolsillo porque sabiendo desde el principio que se les está diciendo

se está invadiendo la normativa de la competencia europea quien persiste en ello digamos que alguna responsabilidad personal tendrá que tener en esta materia

nosotros hemos defendido siempre que se apliquen los convenios colectivos siempre lo que no entiendo es por qué usted defiende

estamos hablando de que hay una normativa que dice que todas las empresas guipuzcoanas aunque no lo tengan y sí tengan convenio colectivo tienen que tener aplicado

de gipuzkoa que todas las empresas vizcaínas no tienen que aplicar el de bizkaia tienen que aplicar el de gipuzkoa para poder licitar las alavesas las europeas

y esa norma está para defender derechos laborales o está para excluir a todas las empresas y que solo unas pocas puedan acudir a esa licitación porque la sensación que da es esa

si ustedes han venido a hablar de otras cosas solo le voy a recordar

derecho de la competencia es para beneficiar a los consumidores lo que se garantiza son los derechos de los consumidores

mediante multas que impone la autoridad de la competencia y se garantiza frente a las administraciones

que vulneran esos mismos principios eso es el derecho de la competencia aparte de que como usted sabe una de las cosas y uno de los principios básicos

y esto de pretender ponerle corrales al campo pues está muy bien pero la utilidad puede ser poca o ninguna eskerrik asko damborenea jauna

señorías lehendakari consejera buenos días bien con brevedad puesto que hemos alcanzado un

interesante importante en relación con la implantación la progresiva implantación del procedimiento de mediación en la comunidad autónoma vasca voy a leer primero la enmienda de transacción como el acuerdo básico

de la importancia de esta cuestión la enmienda de transacción dice que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a consolidar los procedimientos de mediación intrajudicial implementados

en el resto de las jurisdicciones en el plazo de seis meses dice también que asimismo el parlamento vasco insta al gobierno vasco a realizar actuaciones dirigidas a visibilizar y divulgar la existencia de tales servicios y el procedimiento alternativo de resolución de conflictos como es la mediación en el ámbito extrajudicial y dice

que trabajan en el derecho colaborativo e insta al gobierno vasco a proseguir con las actuaciones de promoción y fomento del derecho colaborativo hasta ahora desarrolladas es decir mediación intrajudicial extrajudicial derecho colaborativo importantes cuestiones a desarrollar

es realmente ventajoso este sistema son realmente ventajosos estos sistemas pues lo decía recientemente un conocido penalista criminólogo permitirá resolver

manera más rápida incluso en el ámbito penal destacaba también este penalista que además será incluso diez veces inferior

ciudadano que un pleito ordinario en relación con estas cuestiones yo creo que es una importante contribución desde la unión europea

décadas un profundo impulso en favor de la promoción de instrumentos alternativos a la resolución de conflictos como es el procedimiento de mediación la directiva

de mediación en asuntos civiles y mercantiles van en ese sentido la importancia de la directiva deriva de su objetivo

el acceso a modalidades alternativas de resolución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada

cinco barra dos mil doce de mediación en asuntos civiles y mercantiles

sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles sino que por primera vez en nuestro país se establece un régimen general

de conflictos privados también efectivamente el gobierno vasco esta moción en consecuencia de interpelación ha anunciado una apuesta del gobierno vasco por la consolidación de los instrumentos y servicios de mediación existente hablamos de un procedimiento destinado a inculcar a la ciudadanía el valor del diálogo

de la mejora de las relaciones personales e institucionales sin olvidar el

un conflicto sin necesidad de llegar a un juicio a pesar de estar hablando de un procedimiento que supone un ahorro de tiempo

respecto a los procesos judiciales a día de hoy prevalece entre la población desconocimiento

sin olvidar algunos recelos de algunos sectores de la abogacía pero también los abogados pueden encontrar

mediación intrajudicial extra judicial del derecho colaborativo y yo creo que

apuesta por los valores de humanización y modernización de la justicia también en el país vasco la calidad de la justicia pasa forzosamente por la

que se encarguen de aquella litigiosidad considerada impropia es decir aquella que nunca tuvo que llegar a los tribunales o que por sus características necesita de métodos de resolución diferentes al método tradicional judicial es necesario aumentar la conciencia social de la utilización de la mediación ello redundará sin duda

y vendrá acompañado de una mayor satisfacción en la resolución de conflictos comunidades autónomas otras han sido pioneras en la apuesta firme por este procedimiento prueba de ello es la legislación desarrollada además

la mediación a otros tantos conflictos entre las personas sin olvidar las campañas de difusión puestas en marcha incluso proyectos piloto con soporte institucional introducción de la obligatoriedad por categorías de asuntos o tareas de conflictividad el elemento imprescindible para que avance la mediación

a través de su difusión y ahí es donde el gobierno vasco debe de hacer un esfuerzo de información y de difusión indirecta

directa en relación con la implantación de elementos a través de instituciones varias que puedan difundir

estas cuestiones es decir en otros sitios juzgados de paz el ararteko la policía local la ertzaintza pues también la labor de difusión o de información puede estar ahí lo importante desde luego es que la gente conozca la existencia de la mediación

el hecho de que los ciudadanos se acerquen a la mediación es lo que auspicia que con el tiempo cada vez

además para las partes en esta labor de concienciación y difusión de la mediación por eso el gobierno vasco no solamente no puede quedar al margen sino que se tiene que involucrar es necesario una difusión de la mediación entre la ciudadanía vasca que enfatice tanto los beneficios para la mejor gestión de los conflictos como sus aspectos técnicos y será necesario el diseño de estrategias de comunicación generalistas y lógicamente también entendiendo que se debe de continuar la tarea ya iniciada en ese sentido

ver con optimismo el panorama que en relación con el procedimiento de mediación o del derecho colaborativo se abre cada día hay más asociaciones hay entidades hay más profesionales involucrados no solamente teóricamente sino prácticamente en arreglar los conflictos por estas otras vías alternativas

felicitarnos por el acuerdo alcanzado y agradecer fundamentalmente al señor zorrilla y a la señora gallastegui su colaboración

duelako herritarra arduratzeko beste erreminta inportantea traía como digo un discurso amable para una herramienta eficaz como es la de la mediación ante agravios pleitos ante conflictos

cuando verificaba que las posiciones de los grupos no eran demasiado diferentes y podían fácilmente confluir en una transaccional más aún cuando entendía que el interés más allá de ese interés de cualquier de que salga su propuesta era el interés de que esta cámara de una forma unívoca con la mayoría posible de esta cámara se posicionara

un mensaje en términos positivos a los profesionales a las asociaciones que impulsan el derecho colaborativo un impulso para que la ciudadanía descubra una oportunidad real

de esta forma efectiva como digo venía con buenas intenciones buenas intenciones trituradas por el ejercicio de infantilismo

no hay insalvables diferencias de fondo pero nuevamente nos quedamos en una cuestión de mera pose de mera forma no se firman transaccionales con eh bildu algo a lo que me niego a acostumbrar sin al menos

que pueda estampar mi firma aun estando a favor de la transaccional que se propone trae el tema nada más y nada menos la mediación para la resolución de conflictos señor barrio así predicamos con el ejemplo con la propuesta que nos trae vende consejos

que para usted no los tiene cómo entiende

que no puede encararlos porque cierto es disidente con ustedes en muchos puntos pero no en este no en el actual qué mensaje envía a todas esas personas a todas esas asociaciones a todos esos

que impulsan la mediación el derecho colaborativo la resolución de pleitos por medio del entendimiento una vez expulsado del grupo

qué debemos hacer actúo en responsabilidad y con apego al esfuerzo de los profesionales de este sector o por principios y por coherencia

ustedno me ha permitido participar no es algo en balde señor barrio porque se supone que lo que usted estaría buscando es

que es importante que es trascendental qué hago para dar una patada

de todos esos ciudadanos que se interesan por esta herramienta repito es

esta actitud de política de niños en términos generales con cualquier tema pero más aún cuando usted nos acaba de pregonar las bondades de la resolución de conflictos interpartes por vía del sistema de mediación

a eh bildu en este consenso había diferencias entre las propuestas que traíamos

porque efectivamente en el pleno de control aquel en el que se debatió la interpelación del señor barrio

se constató que por lo menos de manera teórica y parece que también de manera práctica

a la valoración de la mediación como una herramienta eficaz para la resolución de conflictos complementaria a la administración de justicia o incluso fuera del ámbito estrictamente judicial y la verdad es que son muchas las ventajas que proporciona el sistema de mediación y que con seguridad

voluntariedad gratuidad oficialidad flexibilidad bilateralidad

decisión de las partes y en la intervención de un mediador del que se pretende una intervención activa propositiva

ese régimen de la mediación tiene su fundamento en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad expresada en el acuerdo que la pone fin

bien mediante su elevación a escritura pública o bien mediante su homologación judicial si el proceso de mediación se inició una vez ya judicializada la litis

debemos favorecer pues esta alternativa frente a la solución

o pérdida del papel fundamental central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son

es siempre siempre la solución perfecta cuando estamos hablando

de los que podemos disponer abundando y si hacemos una remisión expresa a la ley de mediación civil y mercantil la mediación coadyuva al alivio de la carga de trabajo de jueces y tribunales y de manera tangencial el gasto que produce el propio sistema judicial y efectivamente esos efectos se producen pero como expresamente reconoce la ley de mediación no es lo más importante aunque también es muy importante y no tenemos nada más que remitirnos por ejemplo a las manifestaciones de ayer

de limitación del derecho al acceso a la justicia de todas esas cosas de las que venimos hablando

que están mermando la tutela judicial efectiva y que de alguna manera y de forma colateral la mediación evita

en definitiva señorías las partes se convierten en actores y guionistas

que voluntariamente adoptan da un plus añadido a la satisfacción de las pretensiones y también minoriza

muy muy importantes cotas de reducción de problemas de ejecución por eso hemos firmado esta enmienda transaccional vuelvo a repetir que me quedo con el acuerdo y con el apoyo en la que se somete a consideración del pleno y esperamos que por lo visto ya esperamos no ya tenemos claro que parece que se va a aprobar

coincidimos efectivamente como decía en todas las bondades del sistema de los beneficios tanto directos como colaterales en esa cultura del diálogo de empatización

señorías y hay que decirlo es que hasta ahora no ha habido muchos pasos adelante en este asunto por parte

se han dado muchas noticias en relación a la mediación a la valoración del setenta y nueve por ciento de porcentaje de resoluciones estupendas en fin todas estas cosas pero al final al fin y al cabo de lo que se trata es de que

haya alguna iniciativa en este sentido y este es el objetivo fundamental

primera de la enmienda que hemos firmado

a partir de ahora lo que esperamos es hechos y además

un servicio de mediación en el que se están poniendo en marcha iniciativas agradecer a todas aquellas

asociaciones iniciativas que parten y van poniendo los

colaborativo nada más y muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea

lankidetza sustatzea es por ello que compartimos las virtudes y bondades que se han mencionado de la mediación como sistema alternativo para la resolución de conflictos al margen del procedimiento estrictamente judicial mostrándose

en los que las partes necesariamente tienen que relacionarse en el futuro o en las que las relaciones futuras sean convenientes para ambos en cualquier caso la resolución del conflicto a través de la mediación supone que ambas partes van a salir ganando frente al esquema clásico del enfrentamiento contencioso en el que va a existir una victoria y una derrota judicial se van a ver desestimadas pretensiones de ambas partes con la consiguiente insatisfacción

en una solución auto compositiva como se ha dicho es decir que las partes solucionen el problema por sí mismas y entre ellas mismas con la única colaboración

coincidimos en que es necesario que desde las instituciones públicas se centren los esfuerzos en poner en valor la mediación para que esta sea percibida por las partes como un método que pueda resultar más adecuado que el proceso para dar solución a determinados conflictos básicamente por tres motivos que más o menos se han mencionado en primer lugar

en segundo lugar porque favorece el cumplimiento de lo que se acuerde al haber sido consensuado entre las propias partes implicadas y en tercer lugar porque reduce el coste emocional y económico que supone para el justiciable del proceso judicial también colateralmente como se ha mencionado

y consecuentemente disminuir esta disminución de trabajo puede producir una reducción del coste judicial pero dejando al margen estos aspectos puramente economicistas que también son positivos la principal virtualidad de la mediación entendemos que es en dar una respuesta más satisfactoria

de la calidad del servicio a la ciudadanía y en este respecto hay que decir que mientras en el estado español

sobre mediación y asuntos civiles y mercantiles a través de la ley cinco barra dos mil doce de seis de julio de mediación y asuntos civiles y mercantiles en euskadi en la comunidad autónoma

por esta fórmula autocompositiva viene de lejos se inició mucho tiempo atrás y ha sido y es pública y gratuita el servicio de mediación familiar se instauró en el año mil novecientos noventa y seis en bizkaia y en la actualidad es un servicio

y atendido por un equipo profesional interdisciplinar integrado por profesionales expertos en mediación familiar y está regulado

en dos mil siete se implantaron los primeros servicios de mediación penal dependientes en aquel entonces de la denominada dirección de ejecución penal como experiencia piloto en el partido judicial de barakaldo y de gasteiz y desde el año dos mil once el servicio de mediación intrajudicial

por lo tanto pueden derivar asuntos todos los juzgados del orden jurisdiccional penal incluidos los juzgados de menores y los de familia en el orden jurisdiccional civil hipoteka bitartekaritzako

pasa por el desarrollo de mecanismos alternativos para la resolución

o expresiones de justicia restaurativa como es el caso de la mediación y fruto de este convencimiento hoy en día podemos afirmar que euskadi está a la cabeza de la mediación en el estado español

usaron este sistema al servicio de mediación intrajudicial penal le fueron remitidos durante el pasado año

de los cuales acabaron con éxito el setenta y nueve por ciento de los casos cerrados tres puntos más por encima de la media estatal mención especial merece la mediación

en su comparecencia del pasado doce de marzo al presentar la evaluación

en dos mil trece se realizaron un total de trescientos ochenta mediaciones de las cuales el noventa por ciento finalizaron con acuerdo entre las partes

un cincuenta y dos por ciento de los casos cerrados acabaron con acuerdo también

que se sitúa en un cuarenta y ocho coma ocho por ciento en el ámbito de la mediación familiar extrajudicial además de constatar un considerable

hay que destacar que en el ochenta por ciento de los casos se llegó a un acuerdo entre las partes evitando la judicialización del asunto

el servicio de mediación hipotecario del gobierno vasco gestionó durante el año dos mil trece un total de cincuenta y ocho mediaciones y de los expedientes que constan como cerrados

consiguió llegar a un acuerdo por ambas partes por lo tanto queda meridianamente claro con datos objetivos cuál es la postura del gobierno vasco en esta materia dejando constancia

y reiterado en esta cámara y en distintos foros de cara a consolidar los instrumentos y servicios de mediación actualmente existentes y procurar su paulatina implantación en aquellos ámbitos en los que aún no está instaurada y en esta línea como decían las personas que me han antecedido en el uso de la palabra va el punto segundo

perdón el punto primero de la enmienda de instar al gobierno a consolidar estos procedimientos de mediación intrajudicial y a presentar un estudio para el desarrollo e implantación en el resto de jurisdicciones en el plazo de seis meses sin perjuicio

contestó por escrito a preguntas evacuadas por la señora gallastegui

que se suspendieron en dos mil once por motivos presupuestarios respecto al segundo punto de instar al gobierno a realizar actuaciones dirigidas a visualizar y divulgar la existencia de tales servicios

pues a pesar de que se mencionaba que hay poco conocimiento y quizás sí aunque vemos que van avanzando estos datos recientemente en el mes de mayo

referidas al balance del ejercicio dos mil trece en distintos medios como el diario vasco el correo deia etcétera por resumir algunos además

grupo europeo de magistrados por la mediación y la audiencia provincial de gipuzkoa una serie de seminarios de trabajo sobre la mediación intrajudicial penal a celebrar en los seis partidos judiciales de gipuzkoa con objeto de llevar a cabo una reflexión sobre el protocolo de funcionamiento del servicio de mediación intrajudicial penal

criterios de actuación que se acomoden a los contenidos de la directiva dos mil doce barra veintinueve del parlamento europeo y consejo de veinticinco de octubre del dos mil doce y poderse aplicar

al resto de las audiencias finalmente el punto tercero de la enmienda transaccional

a proseguir con estas actuaciones de promoción y fomento del derecho colaborativo mencionar que también

una experiencia pionera única en este sentido a nivel del estado español en la formación de los profesionales del derecho para el ejercicio profesional colaborativo de manera que las partes en conflicto con la participación de sus asistencias letradas resuelvan la controversia sin acudir a los tribunales para lo cual puedan utilizar también la mediación por tanto el derecho colaborativo es por ello otro método alternativo de resolución de conflictos

y civil por lo tanto como vemos estos datos denotan cuál es la intención y el compromiso del gobierno vasco y que también que la ciudadanía cada día es más consciente de que este puede ser quizás haciendo

y eso también se refleja en que es la segunda comunidad autónoma que menos procedimientos judiciales tiene después de la rioja a nivel del estado español y esa tradición de pacto hace que nuestros ciudadanos y ciudadanas estén más
si se ponen los medios para llegar a la mediación como solución de los conflictos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda